buenos días señorías con este escrito de oposición al protocolo entre los gobiernos canario y vasco para trasladar menas una vez demostramos otra vez que hemos venido desde vox a cambiar las cosas

y utilizado esta herramienta parlamentaria para denunciar lo que hoy nos ocupa un convenio que no va a solucionar la vida a quienes llegan engañados desde sus países en busca de un mundo mejor y aunque nos vayan a criticar de hecho ya lo han hecho en algunos medios de comunicación esos que les son tan afines

sino permanecer vigilantes a la acción del gobierno por el bien común de todos los vascos y siento estropearles los titulares de hoy pero no se confundan

no va dirigida a los menas que llegan a nuestro país de forma ilegal desde vox no vamos a cargar contra ellos desde vox cargamos contra quienes les animan a venir contra quienes les inducen a arriesgar sus vidas con promesas

estos últimos son los culpables son los gobiernos como ustedes el gobierno vasco los que alardeando de una falta solidaridad atraen a todos estos inmigrantes ilegales dibujándoles un mundo multicolor que nada tiene que ver con la realidad que descubren una vez ponen los pies en el país vasco ustedes les ofrecen un caramelo que solo es envoltorio sin nada dentro sin soluciones sin planes ni garantía alguna de futuro una golosina amarga que les obliga a echarse a las calles y buscarse la vida por su cuenta y riesgo muchas veces además de manera ilegal y es entonces cuando delinquen cuando ustedes se echan las manos a la cabeza

comienza mucho antes comienza cuando se les invita a conocer las bonanzas del mundo desarrollado a unirse a una sociedad próspera y feliz de cuento de hadas comienza cuando se ofrece papeles de una paga mensual a cambio de nada

pobreza envidia hacia lo ajeno y un instinto de supervivencia que lleva a cometer delitos a robar a merodear por nuestros barrios a sembrar inseguridad en nuestras calles porque los datos están ahí no los pueden ocultar existe una correlación directa y probada entre el aumento de la inmigración ilegal y el incremento de la delincuencia llevada a cabo por estos inmigrantes según el portal estadístico de criminalidad del país vasco

en lo que llevamos de dos mil veintiuno estas infracciones han aumentado un siete coma seis por ciento deteniéndonos en el perfil también los datos son cristalinos el pasado año los detenidos extranjeros superaron en número a los nacionales fueron cerca de tres mil personas extranjeras dos mil novecientos ochenta y dos para ser exactos y de ellos

en lo que llevamos de este año los datos van en el mismo camino todos ellos llegaron embelesados por el efecto llamada de este gobierno

lejos de sus países de sus familias y sin recursos porque la realidad es que el gabinete

de esto no se habla verdad su falso progresismo va más en la línea de ocultar que nunca ha existido ni plan ni intención de insertarlos dentro de la sociedad vasca es más

o a realizar tareas que no se corresponden con su cualificación y sus capacidades no lo dice vox lo dicen las listas de lanbide así están las cosas con este gobierno

a menas llegados a nuestro país de forma ilegal sí ilegal

ocultarlos a la sociedad el país vasco a pesar de su menor densidad de población es una de las comunidades españolas con la tasa más alta de menores inmigrantes ilegales

porque tampoco desarrollan leyes que permitan actuar contra ellos cuando cometen delitos desde vox insistimos

que les invitan a venir y después se desentienden y otra cuestión qué obtiene el gobierno vasco de todo esto porque el gobierno vasco no se va con las manos vacías la firma de este convenio

parte y reparte la hucha entre las comunidades complacientes verdad señora artolazabal

primera distribución de subvenciones directas a las comunidades autónomas para la atención a menores inmigrantes no acompañados el país vasco acoge a quince menas desde canarias recibe

segunda distribución en función del número de menores inmigrantes no acompañados durante el segundo semestre del dos mil veinte es decir quinientos cincuenta y siete menas el país vasco recibe medio millón de euros sacando la calculadora en total solo entre estas dos subvenciones porque hay muchas más el gobierno vasco recauda más de un millón cien mil euros

esto nos lleva a pensar que cada vez sale más dinero del bolsillo de los vascos para estos menesteres por lo tanto dejen de engañar ya a los vascos esto no es una cuestión de solidaridad

y si ustedes tuvieran un halo de humanidad no debían haber permitido que estos menas que han entrado en nuestro país de manera ilegal estuviesen un solo minuto alejado de sus padres estos niños engañados en muchas ocasiones deben ser devueltos inmediatamente a su lugar de origen y permanecer bajo el cuidado y la tutela de sus progenitores no de una institución en un territorio lejano del que jamás habían oído hablar y con el que no guardan ningún tipo de vínculo

invita a la no integración de estos jóvenes entre nosotros ustedes se muestran más respetuosos con sus culturas de origen que con la nuestra propia y eso no ayuda en absoluto y nos hablan de solidaridad

para que estos menas vuelvan con quien deben estar para que vuelvan con sus padres solidaridad es atender a nuestros jóvenes que se encuentren en situación precaria porque no encuentran empleo

solidaridad es ayudar a todos los vascos apuntados en largas listas de espera para acceder a una vivienda de protección oficial

que esperan para obtener plaza en una residencia y no la reciben en españa hay dieciocho mil niños que viven en orfanatos la mayoría de ellos están condenados a crecer solos

porque la enorme burocracia y las trabas administrativas no promueven su adopción

hasta tal punto es la dejadez de los gobiernos que las familias adoptantes españolas tienen que irse a otros países para poder adoptar

en este convenio con el gobierno de canarias nos hablan de solidaridad interterritorial pero solo con los inmigrantes extranjeros de canarias no con los más de mil canarios que han perdido sus casas y pertenencias en la erupción del volcán cuántas ayudas les ha concedido el gobierno vasco

en aras a esta solidaridad internacional interterritorial para los que han perdido todo en la isla de la palma no espero su respuesta no la hay ni un solo euro

los que ya están y los que vendrán gracias a sus políticas de efecto llamada esta es la realidad son más importantes los inmigrantes ilegales que los propios vascos y españoles

es ejercer un control efectivo de fronteras es ofrecer apoyo para resolver los problemas en el país de origen solidaridad con mayúsculas es velar para que cada niño esté bajo la tutela y protección de sus padres para vox esto es ser solidario todo lo demás

señorías buenos días señora martínez compartimos con usted la preocupación por la situación

complicando también en las fronteras de la unión europea permanentemente se complica

está así sabemos que hay problemas generados por esa inmigración

que pone en riesgo la vida de tantas personas y que tiene tantas dimensiones sociales sanitarias de seguridad y contemplamos también con estupor la situación en que se pone

unas veces gobiernos vecinos otras veces mafias que operan en las costas cercanas

o el engaño o la visión de una europa

que puede tener ese rasgo de atracción lanzan al mar

nuestras costas en este caso concreto las costas de las islas canarias pero conocemos también que hay colaboración

que esta situación está generando en la comunidad autónoma de las islas canarias que desborda

la capacidad política la primera pero la capacidad asistencial

y eso debe de generar una solidaridad en el resto de las comunidades autónomas usted ha mezclado hoy algunas cuestiones pero yo creo que en lo que se refiere a lo que es el convenio la derivada es una y en ese sentido

muchas de las cuestiones que tienen otras componentes y efectivamente en algunas de las cuales la preocupación que usted manifiesta es cierta pero que yo creo que tenemos que operar

ese sentido de la comprensión de la colaboración de la solidaridad además tengo que decirle que el país vasco no va a ser la primera comunidad que responda a la llamada de auxilio de canarias han sido otras también las que han respondido ya a las necesidades de acogida que se han producido en canarias o antes se produjeron

probablemente todas las que hayan respondido a esas llamadas de auxilio y de colaboración y usted manifiesta una preocupación pero no creo

con todo el cariño que el planteamiento de oposición que usted nos presenta sea el mejor nosotros no lo compartimos si una comunidad autónoma española

pide colaboración para un problema tan importante como este

darle la espalda y decir que ahí se las componga efectivamente nosotros podemos ver al gobierno de españa paralizado muchas veces desconcertado porque tiene muchas de las capacidades que usted atribuye al gobierno de canarias y que el gobierno de canarias no puede gestionar

paralizado y desconcertado pero algo hay que hacer y algo tenemos que hacer los españoles cuando hay un mensaje de auxilio o una llamada

y no es tan fácil señora martínez como usted pide coger a los menores y devolverlos a sus padres a sus países de origen y menos que eso lo pueda gestionar ni prácticamente ni jurídicamente una comunidad autónoma esas actuaciones corresponden al gobierno de españa efectivamente no puede ser usted ahí confunde también en parte de lo que

para descalificar el convenio la posibilidad de actuar por el gobierno de las islas canarias y eso no es posible no lo puede hacer

nosotros hemos podido informarnos de cómo están respondiendo otras comunidades y otros ejecutivos y vemos que están respondiendo a esa llamada de auxilio que por ejemplo castilla león ha firmado un convenio por veinticinco menores que extremadura también que galicia ya tiene acogidos a quince canarias antes los ha habido con los de ceuta que cantabria madrid

algunas además como andalucía son receptoras permanentes de personas no acompañadas que vienen a través del estrecho a sus costas

determinadas actitudes de algunas de las personas que vienen

a la ciudadanía y evitar esas situaciones de inseguridad es una responsabilidad de los departamentos de seguridad de interior de las distintas administraciones

por eso usted yo creo que confunde determinadas cuestiones en este escrito de oposición al convenio y sobre todo vuelvo a decir cuando usted habla de que el gobierno de canarias debería estar más preocupado y centrado centrando todos sus esfuerzos

con sus familias en vez de ver cómo los recoloca y dispersa en el territorio nacional con la directa connivencia de las demás comunidades autónomas yo le tengo que decir

yo le diría dos cosas básicamente con este tema que el gobierno de canarias no puede hacer eso que usted le pide no lo puede hacer prácticamente

supongo que se la pedirá mucho más insistente que a las comunidades autónomas al gobierno de españa supongo que será mucho más insistente

le tenemos que hacer caso y le tenemos que echar una mano en este caso y desde luego lo que usted llama connivencia no es connivencia

que hacen las comunidades autónomas sabiendo que les cuesta que les genera también

a solucionar un problema por eso estas son las razones por las que mi grupo se opondrá a su escrito de oposición muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

gracias señora presidenta señor barrio efectivamente nosotros no criminalizamos a los mena lo hemos dicho desde el inicio de la intervención
culpamos de ello tanto al gobierno vasco como al gobierno de madrid creo que eso ha quedado

llevan tiempo además haciendo un efecto llamada y vendiendo los mundos de yupi a toda la inmigración llegan estos muchachos y además es lo que nos preocupa que llegan de forma ilegal nosotros estamos de acuerdo en la inmigración claro que sí

legal y ordenada y no ilegal y desordenada creo que eso es fundamental para cualquier sociedad democrática que se precie de ello

en aquel sitio en el que estuviesen se pusieran en contacto conmigo y me los devolviesen creo que eso es fundamental para cualquier padre

en un centro de acogida en el que prácticamente no se les presta ni apoyo ni ayuda es cierto que ha dicho usted que esto es algo que se recoge en un convenio y que todas las comunidades lo aceptan pero creo que en madrid en una comunidad en la que hay muchísima más población que la que hay aquí en el país vasco el número de mena es infinitamente inferior algo tendrá que ver todo esto

les llaman un parlamentario de esta cámara dijo públicamente en un medio escrito si al pnv no les gustan algunas cosas que digo a mí tampoco algunas de las que dicen ellos y eso en el juego político y en democracia es normal lo dijo un parlamentario de esta cámara no voy a decir quién porque él ya lo sabe

y diga lo que piensa pues señorías eso es lo que hay a ustedes no les gustarán cosas que dice vox pero a vox hay muchas cosas que no les gustan y que ustedes dicen y tampoco entendemos pero ya lo saben como decía este parlamentario en el juego político y en democracia

piensa así que aunque no les guste mucho lo que hemos dicho y estén ustedes en contra pienso que el respeto es fundamental gracias eskerrik asko martínez andrea

una serie de medidas como si fueran unas medidas claves para garantizar la imparcialidad

la transparencia del proceso dotar a los tribunales de un manual operativo cuando ha habido manuales operativos

y pudimos contrastar cuando analizamos y leímos las actas en la sede central

que ese manual operativo no se ha respetado y además no se cumplió con el permiso y beneplácito

leyendo las actas además en respuesta a la interpelación

que no van a dejar de lado al ivap y a la vez en la mesa de negociación se afirma que no van a contar para nada con el ivap contradicción

no se entiende que no se cuente con el ivap para preparar los exámenes tipo test

y se diga como se nos dijo en la interpelación que el tribunal tendrá la opción de encargar la elaboración del examen a una estancia ay perdón a una instancia externa con experiencia y conocimiento en esa materia es decir tenemos un instituto

formar estas cuestiones con la administración y no contamos con ella y se prioriza

que no sabemos cuál es por cierto y además se deja a la discrecionalidad de cada tribunal se plantea evitar que una única persona sea conocedora y sea la que diseñe el examen el contenido final del examen

pero no ayudaría a la trazabilidad que el que diseñe el examen sea una única persona

así como los derechos y obligaciones de los integrantes de los tribunales hasta ahora también existía ese acuerdo ese código y qué es lo que ha pasado

gurpil biziatu eta o pasas por el aro

o pasas por el aro o te jubilas eventual bi eredu horiek dira

adierazten dugu el parlamento vasco considera un paso atrás en la búsqueda de transparencia del modelo de ope la decisión tomada por osakidetza para las bases generales de la ope

por la que los propios tribunales de las categorías decidirán quién y cómo elaborarán los exámenes de la propia

garantizando la trazabilidad importante la trazabilidad del proceso

hirugarrena el parlamento insta al departamento de salud a reformular

imparcial que garantice la igualdad de oportunidades la máxima transparencia y la trazabilidad

opositoras para que no se repita lo sucedido en la oferta pública de empleo dos mil dieciséis dos mil diecisiete y en consecuencia

retomen las negociaciones se acuerden con los sindicatos las funciones que debe desempeñar el ivap las nuevas ofertas de empleo de osakidetza para que de esta manera osakidetza no sea una excepción en la administración de la cav

el ivap en las ofertas públicas de empleo en el resto de los ámbitos

ubera que esta moción se debate aquí a posteriori

convocatoria de la ope y de la decisión del gobierno vasco de plantearla

elkarrekin podemos izquierda unida comparte una decisión que no solo es anterior a esta moción sino que en nuestra opinión desde luego parece ser que es anterior también al día en el que la señora ubera interpeló a la consejera que

que el gobierno tiene una puerta abierta a esa negociación y esta es la primera cosa sobre la que mi grupo desde luego quiere llamar la atención

los representantes las representantes de las y los trabajadores de osakidetza

pasen por aquí o si quieren no pasen y demasiadas veces hemos visto que ese es el concepto de negociación de este gobierno con las centrales sindicales

en las comisiones de este parlamento han llamado la atención sobre esta cuestión sobre que el gobierno sí muchas veces informa se sienta en mesas el gobierno pone en valor muchas veces esas propias mesas nosotros compartimos el valor que tienen esas mesas pero luego vemos que la realidad es que se usan de esta manera

llamar la atención una cuestión importante sobre la que se debería haber negociado que

que estas ope se convocasen con un acuerdo con los sindicatos que tenían no solo voluntad sino propuestas concretas y sin embargo hemos visto que la ope se convoca de una manera unilateral y sin tener en consideración

los sindicatos y en el fondo de la cuestión pensamos que esto demuestra una falta de voluntad de este gobierno para evitar las dudas las sospechas sobre posibles filtraciones sobre posibles irregularidades en una cuestión tan importante como las ofertas públicas de empleo

con los antecedentes que tenemos con el escándalo mayúsculo que supusieron

ope un escándalo mayúsculo que no se puede negar más allá de

los tribunales el escándalo es mayúsculo lo conoce todo el mundo costó el puesto a altos cargos del gobierno costó el puesto al consejero al señor darpón lógicamente

de índole laboral ya está perfectamente colocado en keralty

ese no es el problema no se puede negar que fue un escándalo

y que puso sobre la mesa las debilidades del modelo de cómo se estaba haciendo y que eso era lo que había que corregir y la decisión que ha tomado el gobierno con estas ope

del modelo anterior y esa es la crítica fundamental que hemos podido oír estos días concretamente a comisiones obreras y a ugt

que mantiene lo fundamental del anterior modelo mantiene aquello que incluso por parte de la fiscalía decía que era donde se

de los exámenes mantener el peso de las pruebas en los tribunales no es una buena decisión y no se modifica lo que

sobre aquellas ope sobre el papel del ivap si el gobierno dice

creo que ha tenido tiempo el gobierno desde los escándalos de esas ope

no tiene capacidad técnica para hacer lo que debería hacer será obligación del gobierno capacitar al ivap para que pueda hacer esa labor y finalmente no me voy a extender la situación del empleo en osakidetza todas y todos sabemos

que no es la mejor está plagada de problemas por supuesto la altísima temporalidad la mayor temporalidad

producto de muchas políticas no solo de las tasas de reposición a las que creo que hacen referencia

al gobierno problemas de índole laboral con todas las subcontratas

por este parlamento y por lo tanto el debate desde luego para nuestro grupo

nosotros queremos dejar bien claro esa posición ope hacían falta y efectivamente como dice la enmienda de los grupos que sostienen al gobierno

pero había que hacer bien las cosas porque tenemos una situación singular

producto de aquellas ope irregulares que hubo en la anterior legislatura y no se han puesto las herramientas para corregir eso y por lo tanto

lo fundamental la trazabilidad de los procesos y sobre todo sobre todo que las personas que van a participar en esas ope tengan la confianza recuperen la confianza perdida tras aquellos escándalos anteriores

el gobierno ha tenido tiempo de poner las herramientas para corregir esto y no lo ha hecho y en el último momento

demostrando una vez más su falta de voluntad negociadora con las y los representantes de los trabajadores por lo tanto nosotros

en esta propuesta que trae la señora ubera hemos transaccionado con ella porque pensábamos que había que hacer dos cosas primero esto incluía en la enmienda que nosotros hemos presentado pensábamos que era de recibo que este parlamento hiciera ese tirón de orejas al gobierno vasco sobre lo que ha supuesto lo que supone esta decisión y luego

modo más propositivo desde luego instar al gobierno a dar esos pasos para que estas cuestiones se vayan corrigiendo y modificando y que se acuerde con las centrales sindicales que ya han puesto las propuestas sobre la mesa las propuestas ya las conocemos por eso nosotros las incluíamos ya directamente

creo que compartido por todos en esta cámara es que las irregularidades cometidas o detectadas

no se vuelvan a repetir y que señalar que sin duda asistimos con esas irregularidades a un capítulo negro en la historia

más valoradas por la ciudadanía vasca numerosas filtraciones de los

que obviamente llevaron injustamente y no respetando los principios inherentes a un proceso selectivo público que determinadas personas

que no les correspondían hemos tenido también la posibilidad de tratar este tema de estudiar este tema con comparecencias con informes específicos del

de la universidad de oviedo hemos tenido también un documento final con propuestas a las que se ha hecho referencia con medidas

para aplicar en los futuros procesos selectivos

o las irregularidades mejor dicho que se produjeron no se vuelvan a repetir hay que decir que las consecuencias de las irregularidades en el ámbito político las conocemos todos obviamente conllevó a

del director de recursos humanos y del propio consejero el señor

es necesario y en esta nueva ope que se vislumbra establecer las garantías precisas de transparencia e imparcialidad en los procesos futuros selectivos lo que no puede volver a pasar es que asistamos al espectáculo que asistimos en la ope de dos mil dieciséis dos mil diecisiete cuando el propio consejero el señor darpón además nos decía que se

pues nada más lejos de la realidad desde luego la situación de osakidetza es delicada en cuanto a los recursos humanos

que tiene el servicio público de salud y yo añadiría también las necesidades

por las jubilaciones que se van a producir en ese sentido no me voy a detener las tenía también para citarlas pero como

las treinta y siete medidas correctoras que se quieren implantar en futuras ope están ahí y lo que queremos es instar al gobierno y así lo hemos hecho en nuestra enmienda de totalidad

medidas que sean necesarias para que se cumpla estrictamente la legislación vigente como no podía ser de otra forma tanto en las cuestiones procedimentales como la composición de los tribunales

para garantizar como decía anteriormente los principios de igualdad mérito y

pública con una especial referencia a la imparcialidad

para que no se repitan las numerosas irregularidades en la ope tenemos una enmienda de transacción tengo que decir que no he participado en esta enmienda de transacción

no nos vamos a oponer a ella coincidimos con algunas

que se plantean en la misma y otras sí que es cierto que las matizaríamos en alguna

compartimos el objetivo de que se hagan las cosas bien en cuanto a la enmienda presentada por los grupos que apoyan al gobierno tengo que señalar

y que se garanticen los principios de igualdad mérito y capacidad es algo obvio y

en contra pero sí que creo que este gobierno tiene una responsabilidad en esta ocasión

si cabe aún sobre todo la responsabilidad añadida de no sembrar ningún tipo de duda en relación

que está encima de la mesa ni de futuras ope sobre todo para que no se repitan como decía lo sucedido en la anterior ope

aspirantes que vieron sus legítimas aspiraciones truncadas por filtraciones y en definitiva porque no asistimos a un proceso para nada limpio

en la gestión del gobierno del señor urkullu la pasada legislatura esperemos y estaremos vigilantes para que

ofertas públicas de empleo que se convoquen por parte del gobierno así como en este caso por parte

gracias señora presidenta los socialistas vascos estamos comprometidos con el cumplimiento de la ley

selectivo en el sector público en cualquiera principios como los de igualdad mérito capacidad transparencia objetividad y fiabilidad

de los procesos selectivos en cualquiera de las ope de las administraciones públicas y hay que aclarar me parece importante que eso no es negociable es decir es algo exigible y que se debe garantizar como no puede ser de otra manera por encima de otros factores coyunturales como puede ser que exista acuerdo o no con la representación sindical sobre las bases de la ope porque los socialistas a los socialistas también nos gusta que las cosas se hagan con consenso y negociando con el ámbito sindical pero que nadie se equivoque porque aquí

y yo creo que es importante recordarles recordarle a la ciudadanía algo tan sencillo como que se pueden negociar muchas cosas pero el cumplimiento de la legalidad

jamás y por supuesto no ha estado nunca la ley se cumple y punto y el que no la cumpla que dé explicaciones ante la justicia ni más

aquí por algunos grupos creo que va a ser necesario empezar por recordar lo más obvio en el caso concreto de la aprobación de las bases generales de la

yo creo que a nadie se le oculta que el escenario idóneo hubiera sido el de lograr el acuerdo en la mesa sectorial

no ha sido así y yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio de corrección de esta situación a futuro porque el acuerdo siempre es lo deseable pero lo cierto es que en esta ocasión no se ha conseguido el acuerdo y entonces qué entonces qué es lo que hay que hacer

esa es la primera pregunta que tenemos que responder y resulta que en este caso concreto las más de tres mil plazas a convocar son como ustedes saben la suma

el número de puestos que han quedado vacantes por jubilaciones por fallecimientos así como una serie de puestos de nueva creación y resulta que por la normativa vigente ustedes lo conocen

se pierden para siempre se pierden para siempre cuál es la alternativa si no se convoca

no verdad yo creo que nadie quiere decir eso pero es que a veces aquí hay gente que se sube y se olvida de las consecuencias de las decisiones que no se toman

pero luego se olvida de las consecuencias de las decisiones que no se toman por lo tanto parece evidente que si no se convoca y se pierden las plazas y no queremos perder las plazas pues hay que convocar la ope bien pues convocada la ope siguiente paso

una mirada hacia cuál tiene que ser nuestro papel correcto pero en este caso concreto no hay acuerdo con los sindicatos qué modelo de proceso de selección tenemos que seguir

aun está en los juzgados alguno de sus términos en este parlamento hubo un gran debate sobre esta cuestión

y en octubre de dos mil diecinueve el departamento de salud presentó este documento que conocemos todos este documento que se titula nuevo modelo

de selección con treinta y siete medidas integradas en cinco ámbitos pues bien lo razonable a nuestro juicio es que el modelo de referencia sea este

y si lo analizan si analizan lo que se ha anunciado lo que conocemos

porque mire vamos a dejar fuera las medidas que son de carácter normativo las medidas de carácter de planificación o generales la uno a la catorce y vamos a centrarnos en las más concretas y donde parece que debe estar el

les oigo que serían las referidas al ámbito de los tribunales y la composición y las referidas a los

a analizarlas una por una porque yo aquí oigo críticas muy generales pero luego nadie baja a lo concreto

y a un espectador medio le debería llamar bastante la atención las referidas al ámbito de los tribunales y su composición de la quince

se cumplen todas todas de dimensionar los tribunales de ocho pasan a seis miembros lo saben selección por sorteo y por criterios objetivos se ha indicado la titulación y los años de experiencia y la aceptación de la condición de miembro del tribunal va a ser obligatoria

los protocolos detallados y objetivos un código de conducta que todos van a tener que firmar y un compromiso ético y que recibirán formación específica para ello

y la misma titulación que la exigida para la categoría díganme cuál es la que no se cumple

me gustaría que la concretaran las referidas a los ámbitos de los exámenes de la veinticuatro

que ya se van a contemplar cuando se elabore el manual operativo como se dijo disponer de un marco metodológico medida veinticuatro

medida veintiséis que se introduzca un elemento al azar en la corrección final de las pruebas

y que la corrección se encomiende al menos a tres miembros del tribunal medida treinta seguimos

medida treinta y uno parece por lo tanto que el problema no está ahí que ya solo nos queda analizar cinco medidas recuerdo el resto se cumplen todas

la primera las referidas a disminuir el peso de las pruebas teóricas en relación con los profesionales especialistas residentes

a las de los conocimientos teóricos y estas dos no se van a poder incluir en el proceso sí pero por qué porque hay un acuerdo de la anterior ope con los sindicatos que establece que se puede guardar la nota para esta de dos mil dieciocho diecinueve

cómo me lo pueden decir me lo pueden decir díganlo

en el ivap y a mí esto me desconcierta profundamente lo digo de verdad

me lo pueden aclarar en primer lugar ya se ha dicho que el departamento lo ha pedido el ivap es decir no es por parte del departamento que no se haya querido

para hacer los exámenes test pero sí va a estar en el proceso dice la señora ubera ha dicho que no se va a contar

es que el ivap es miembro del tribunal el ivap

es que no es posible es que lo que ha dicho no es cierto no es posible al artículo treinta y uno de la ley de función pública no hay más que decir la misma ley

pública lo indica en su primer párrafo

no lo tiene por qué saber pero sí lo saben ustedes el tribunal tiene plena autonomía funcional y eso lo sabemos todos nosotros es decir le podremos aconsejar que acuda a un organismo determinado a la hora por ejemplo

pero el tribunal puede decidir hacer caso o no ustedes se imaginan qué dirían si un tribunal decide

para decirle no haga esto haga esto otro qué es lo que diría qué es lo que diría

y cuarta razón que me desconcierta ustedes conocen saben que el ivap no tiene expertos de todo el ivap recurre a expertos en otros ámbitos

y aquí y aquí como se ha anunciado a los propios miembros del tribunal se les va a indicar ese mismo camino es decir el resultado final va a ser el mismo

por lo tanto y con esto voy a acabar yo creo que no hay ninguna duda en que el ámbito idóneo de esta ope hubiera sido el acuerdo y conseguir el acuerdo

para próximas ofertas públicas de empleo pero sin acuerdo tenemos que tomar una decisión sacamos esta ope

plazas si sacamos la ope que es la decisión que hemos tomado porque no estamos dispuestos a perder más de tres mil plazas para osakidetza qué modelo utilizamos

a este parlamento para evitar cuestiones como las que ustedes han mencionado y ese modelo hoy se cumple por lo tanto yo creo que podrán inferir muchas cosas estamos de acuerdo en que

pero que del desacuerdo con los sindicatos se hiciera la ilegalidad
yo lo siento pero no creo que se pueda gracias eskerrik asko rico jauna

dituen osakidetzak egindako proposamena ez onartzera en ese sentido señor hernández no sabemos quién ha dicho lo de

son quienes vayan a componer los tribunales son los órganos selectivos a los que tanto el estatuto básico del empleado público como la ley de función pública vasca como ha recordado también el señor rico

encomiendan entre otras la función principal de elaborar y corregir los exámenes pero es que no solo es un requisito legal el informe del ararteko

subrayaron la importancia de los tribunales y la necesidad de respetar su autonomía funcional y señalaron que era necesario volver a empoderar a los tribunales en cambio vosotros de entrada

y en la que habéis acordado habéis transado con el grupo eh bildu

que los exámenes lo haga el ivap sin que participe nadie que tenga relación con osakidetza

por si acaso eso es lo que está diciendo en la enmienda si no repasad el texto literal y es lo que venís a decir que nadie tenga relación o que sea ajeno a osakidetza lehen ere

sí a mí me llama la atención sobre todo una cosa del debate se nos dice por parte del señor orbegozo sobre todo

que ponemos bajo sospecha a las y los trabajadores de osakidetza es decir cuando

parlamentario o dos grupos parlamentarios a través de una transacción desde luego eso es lo que plantea mi grupo parlamentario traen la posición

a las y los trabajadores resulta que estamos sospechando de las y los trabajadores no sé si

nosotros hemos traído en nuestra enmienda lo que están diciendo los representantes de los trabajadores lo que están pidiendo los representantes de los trabajadores

le han hecho al gobierno vasco en relación a la decisión tomada por lo tanto la única manera que tengo yo de entender que nosotros hacemos esto porque sospechamos de las y los trabajadores es que ellos mismos sospechen de sí mismos

los trabajadores lo que han planteado son medidas para que se puedan evitar las sospechas de filtraciones que sabemos que se han dado

en el pasado y ustedes han llevado el debate a una cuestión que yo

el señor rico lo ha hecho dice si no hay acuerdo hay que convocar la ope o no

bien yo eso ahí no lo cuestiono en ningún momento en mi anterior intervención ya lo he dicho sí

etcétera ese no es el debate para nosotros nosotros no hemos venido aquí no hemos hecho una enmienda que impugne la decisión de realizar ope sino el cómo se ha hecho el cómo se ha hecho en relación a dos elementos que son los que yo he puesto sobre la mesa

como falta de negociación suficiente con los sindicatos para llegar a un acuerdo y en relación a unos procesos muy concretos que están condicionados por cosas graves que han pasado en el pasado las irregularidades de las anteriores ope y que requerían de un esfuerzo yo creo

para que no hubiera ningún tipo de sospecha de que en este proceso puedan pasar cosas similares en el pasado ustedes han dicho que ha habido cambios

a no firmar ese acuerdo y así se lo hemos oído ese

el problema concreto usted nos pide concreción señor rico el problema concreto

etcétera el gobierno dice es el ivap el que nos dice que no tiene esa capacidad técnica para intervenir de la manera que debería en los procesos de elaboración de exámenes etcétera y nosotros lo que planteamos es que el gobierno sabía que esto iba a pasar el gobierno sabía perfectamente que esto iba a pasar

el gobierno podía haber ido trabajando para que el ivap estuviera en condiciones

se lleva negociando con los sindicatos un año entiendo que el planteamiento de los sindicatos no ha sido del día que el gobierno anuncia cómo lo va a hacer

estaría en la mesa desde el principio y me llama la atención que sobre todo los grupos que sostienen al gobierno o en este caso

primero porque ustedes forman parte del gobierno que supuestamente ha estado hablando con los sindicatos durante ese año y segundo porque entiendo que el grupo parlamentario

y los sindicatos no se han despertado la mañana en la que se reunió por última vez la mesa sectorial y donde después se anunció la decisión por parte del gobierno vasco no se levantaron esa mañana

por lo tanto pues a nosotros nos parece que no se ha querido solucionar esta cuestión y que

va a suponer un paso atrás en relación a esas posibles sospechas para que no se repita lo que ha pasado en ope anteriores y no da garantías de confianza

que se va a presentar a esas ope pero desde luego mi grupo no cuestiona que se tengan que hacer las ope ese no es el debate y es algo que desde luego he querido dejar claro desde mi primera

en relación al señor rico decirle que obviamente claro la ley se tiene que cumplir pero es que en la ope dos mil dieciséis dos mil diecisiete la ley no se cumplió y no se cumplieron los principios inherentes

de selección de estas características un proceso público a los principios de igualdad mérito y capacidad y lo que está claro es que viendo los resultados y viviendo las personas que ocuparon las primeras posiciones en los resultados de

hubo un claro trato de favor y no se respetaron

un proceso limpio y tanto es así que se asumieron responsabilidades políticas o sea

escándalo y se asumieron responsabilidades políticas de primer orden

ceses de la directora general de osakidetza

consejero sí que estoy de acuerdo con usted en que a veces no es posible el acuerdo pero desde luego hay que intentarlo y

claro el que quiera siempre es recurrente esto además en el argumento que usted utiliza

legislatura que no se puede sembrar sospechas sobre los profesionales en absoluto

aquí por no hacer las cosas bien y porque un gobierno no ha hecho las cosas bien lo que se ha sembrado de dudas es la gestión que se hizo de este proceso de selección de la ope dos mil dieciséis dos mil diecisiete de un gobierno

que se velaran por los principios que deben de regir un proceso público como decía de esta índole por lo tanto sospechas por los profesionales ninguna otra cosa es que haya profesionales obviamente que no hayan hecho las cosas bien y en ese sentido este tema está judicializado

tribunales dictaminarán lo que corresponda

es velar por que los futuros procesos selectivos sean absolutamente limpios y transparentes y no haya la mínima sospecha de duda

debate si bien es reiterativo pero sirve para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

gracias señora presidenta yo quiero ser volver a ser

y es que la legalidad y la transparencia no en ninguna mesa sectorial es decir la legalidad y la transparencia se tienen que cumplir en cualquier proceso selectivo sea el de osakidetza sea el de cualquier departamento el de cualquier institución

elkarrekin podemos o el partido popular eso es así la ley está para cumplirla y absolutamente de acuerdo quien no lo cumpla a los tribunales y ojo que los tribunales diriman las responsabilidades y acatemos también lo que digan los tribunales dato que tiene que ser

eso de que han querido dejar los titulares a un lado eso de que el mensaje que se hace llegar a la ciudadanía es peligroso

pues mire esto último estoy de acuerdo el mensaje que hacen llegar ustedes

es muy peligroso porque es una teoría de la conspiración permanente permanente en la que se da una presunción de culpabilidad para todo yo estaría temblando si sale mi nombre en el sorteo de un tribunal en estos momentos y les oigo a ustedes estaría temblando

y eso lo generan con afirmaciones como las que han hecho aquí

y es así nadie ha puesto en duda el papel de los tribunales dice pues lo ha parecido señora ubera lo ha parecido y mucho

y mucho hasta el punto de que a mí me cabe una pregunta

de mi bancada su alternativa cuál es que no haya tribunales cuál es la alternativa

hombre está el artículo treinta y uno de la ley de función pública vasca y fíjese que me he quedado aquí que al final no deja de ser también el porque dice lo mismo

plena autonomía funcional y usted sabe y si no se lo digo pero lo sabe lo sabe

que por la especialidad determinada de una prueba acuda a una asesoría externa y el tribunal

puede decidir lo que crea plena autonomía funcional

el papel el papel del ivap es que se está intentando oiga el departamento ya lo ha trasladado en esta tribuna

con el ivap que el ivap ha hablado de la imposibilidad técnica por cierto ustedes gobiernan ayuntamiento usted sabe que el ivap

pregunte en ámbitos municipales pregunte en ámbitos municipales igual en alguno de los que gobiernan también ustedes

hubo dimisiones hubo no sabemos si pues si no saben no lo diga

si no quiere crear sospechas dice no vengo a crear sospechas pues lo parece y mucho

luego nos decían desde elkarrekin podemos nos decían no es el debate lo de que si no hay acuerdo se tiene que cumplir se tiene que sacar la ope porque ustedes creen y están de acuerdo en que se tiene que hacer bien pero luego me emplea un argumento circular me dice

a ver sí se ha sacado porque no había acuerdo y me critica que se hace sin acuerdo ya es que una cosa es consecuencia de la otra no me sirve de argumento ese argumento circular no sirve no sirve no es real no es un argumento real

usted ha dicho que sí está de acuerdo con que se tenga que sacar la ope porque no quiere que se pierdan esas tres mil y pico plazas y eso lo compartimos y es el coste

desde el partido socialista nos gusta que haya acuerdo con los sindicatos al menos igual que a ustedes

pero cuando estás gobernando y no existe el acuerdo y vas a perder tres mil plazas tienes que tomar decisiones

luego y esto tanto eh bildu como elkarrekin podemos cuando yo les pido concreción me sacan la carta de que el problema es el modelo el problema es el sistema oiga lo del antisistema ya no ya no cuela

del antisistema desde un escaño adecuado compartiendo el consejo de gobierno el gobierno de españa ya no cuela no cuela por lo tanto y con esto acabo señora presidenta creo que de este proceso tenemos que sacar algún deber que otro el primero en todo proceso selectivo el escenario idóneo es llegar a un acuerdo con el ámbito sindical eso es evidente y eso es un deber que a futuro nos tenemos que poner

como la parte de los sindicatos para explorar esos acuerdos pero yo les voy a pedir una cosa si no quieren crear sospechas por favor no las creen
es muy simple no las creen gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak

opes puedan ser elaboradas por el ivap mediante personal ajeno

de manera que se pueda evitar la sospecha de filtraciones hau da si las pruebas las realiza personal que es de osakidetza va a haber sospecha de filtraciones es que es así de simple

es así de simple si me está diciendo usted que está hablando en nombre de los representantes de los sindicatos

es que está reconociendo que los propios representantes de los trabajadores no confían

personal que es de osakidetza va a haber sospecha de filtraciones

de que ustedes han dicho que las pruebas de opes puedan ser elaboradas por el ivap

que más claro no se puede decir nosotros no compartimos esa visión

que está recogido en la normativa básica y en la normativa autonómica

por qué vamos a extender la sospecha de que va a haber filtraciones porque los tribunales se encargan de hacer los exámenes

se hagan por personal ajeno a osakidetza

y no solo eso sino que también dicen que es un paso atrás porque los propios tribunales de las categorías decidirán

quiénes son los tribunales quiénes componen los tribunales beraz guk hor ikusten dugu

gaurko egun honetan gaia berriro ere bai erreminta berri bati buruz doa una nueva herramienta que se va a poner en marcha en el conjunto del estado gracias a la futura ley de vivienda que ya próximamente se debatirá en el congreso de los diputados y de las diputadas

impulsada gracias a las plataformas en defensa del derecho a la vivienda y gracias también

sindicatos de inquilinos y de inquilinas y gracias también a la presión de nuestro grupo parlamentario en el congreso de unidas podemos esa ley va a ver

hacer que no se podía regular en euskadi el mercado privado del alquiler

behar ditu desde elkarrekin podemos izquierda unida hemos peleado en todos los ámbitos en los que estamos para que en euskadi y en el conjunto del estado se tenga una nueva

herramienta que es la de una regulación de los precios del mercado privado del alquiler mediante esta ley se van a poder declarar las zonas de tensionadas del mercado de vivienda

para contener los precios de los alquileres que están en manos también de los pequeños propietarios y lo que es más importante aun se propone también un sistema también

pequeños propietarios bajen los precios de sus alquileres y además además lo que todavía es aun más importante se pueden se van a poder bajar los precios en las viviendas de los fondos buitres y de los grandes

de diez viviendas seguramente a mi coalición y a los grupos sociales

les hubiera y nos hubiera gustado que lo que se va a aprobar en el congreso de los diputados y todavía estamos a tiempo para mejorarlo fuera todavía más allá pero tenemos una realidad que se puede tocar con las manos y que y vamos a tener una nueva competencia en euskadi que va a poder usarse en euskadi para poder declarar esas zonas del mercado residencial

de ley cuando los gastos del alquiler y los suministros básicos superen más del treinta por ciento de los ingresos de las unidades familiares y también donde se den las subidas de precio

de ley por eso en esa interpelación que no fue la primera

pidiendo al gobierno vasco que actuara por eso estábamos pidiendo al gobierno vasco que se pusiera las pilas etxeko lanak egin behar

prezioaren aldeko konpromiso politiko bat y tengo que agradecer en ese sentido al partido nacionalista vasco y al partido socialista de euskadi

que hemos tenido nos parece muy importante que la señal política que salga en el día de hoy es que el gobierno vasco se pone desde mañana a hacer los trabajos que tiene que hacer para poder declarar las zonas de mercado tensionadas del

que se va a hacer en colaboración con las diputaciones forales que se va a hacer el trabajo estadístico que es necesario para luego poder declarar esas zonas de mercado tensionado

de ese acuerdo que se va a tener en cuenta el nivel de ingresos de las familias en base a la renta

los precios del mercado del alquiler que se va a tener en cuenta también la oferta el nivel de oferta de vivienda existente en cada y sobre todo que también se van a incluir los suministros vitales básicos de una vivienda tal y como recoge

la propia ley el propio anteproyecto de ley porque es fundamental que en la determinación de las zonas de mercado tensionado de alquiler incluyamos no solo el alquiler sino también al precio de los suministros

sinatu dugun erdibideko horretan eta horrexegatik poztekoa da vuelvo a decir y reitero que

en cuanto la ley lo permita que va a ser

se pueda poner se puedan declarar las zonas del mercado tensionado del alquiler

a intervenir de una forma directa en el mercado privado de la vivienda regulando congelando y bajando los precios que es lo que este grupo parlamentario lleva años reclamando eskerrik asko

por qué porque ganan una miseria en sueldos precarios que no dan para vivir y mucho menos para pagar los alquileres que están por las nubes mientras algunos se están lucrando

eso que pone en la constitución española también y los titulares en este caso son claros decía el correo hace un par de semanas la crisis hunde a mínimos

una causa clara es la inestabilidad del mercado privado de alquiler que sube y sube y boom hasta explotarnos en toda la cara a las jóvenes pero

las viviendas de alquiler son un lujo y un derecho nunca jamás puede ser un lujo alokairuen kostuak goia jo du errekor guztiak gainditu dira

egun on guztioi efectivamente como bien ha explicado el señor martínez el anteproyecto de ley de vivienda recoge entre otras muchas cuestiones un sistema de control de alquileres que permitirá operar de manera jurídicamente segura en el mercado de alquiler en su versión actual

una pretende recoger el esfuerzo financiero de los hogares para el acceso a la vivienda en alquiler y la otra pretende medir la desviación de los precios de alquiler sobre la inflación

tanto en su vertiente de alquileres declarados por los arrendadores como en el nivel de renta de los contribuyentes cruzando esa información con el catastro de inmuebles

y el esfuerzo financiero de acceso al alquiler a cualquier nivel territorial desagregado esta operación estadística y su difusión pública

que en base a los datos de la agencia tributaria estatal referencias de fianzas de contratos de arrendamiento y de sus propios sistemas de georreferencia ha podido difundir información muy relevante sobre los precios y esfuerzo financiero de acceso al alquiler en dos mil dieciocho

difusión informativa no alcanza a nuestra comunidad autónoma donde la competencia fiscal y de catastro

por lo que para poder aplicar la política de vivienda y la correlativa exigencia de disposición de información estadística válida irrelevante en el tema de

de las administraciones forales el eustat y el propio departamento de vivienda porque el departamento de vivienda dispone de muy amplia y consistente información estadística

en este sentido reafirmamos la disposición a trabajar y a avanzar en la generación de un sistema estadístico válido consistente transparente y accesible a disposición de la sociedad vasca para aplicar las nuevas políticas

que puedan venir y por todo ello nos alegramos del acuerdo alcanzado con el grupo elkarrekin podemos izquierda unida y la disposición del señor martínez a alcanzar el mismo

presentada asentamos las bases del trabajo a desarrollar para permitir dotar a las administraciones públicas y a los agentes económicos y sociales vascos

en cuanto a la moción presentada por el grupo eh bildu como he comentado antes

estatal recoge entre otras muchas cuestiones un sistema de control de alquileres operando sobre sus propias competencias constitucionales

con plena seguridad jurídica para todos los agentes y actores en caso de salir aprobada en términos

un auténtico sistema que permitiría operar de manera jurídicamente segura en el mercado del alquiler por tanto no nos parece eficiente ni eficaz promover una acción legal inmediata para posibilitar el control de alquileres en euskadi con la mínima seguridad jurídica que se requiere en el actuar público

vinculada a la ley estatal de vivienda que parece oportuno y necesario recorrer puesto que permitirá clarificar el marco competencial de las distintas administraciones y las modificaciones legales que van a derivar de la misma por tanto es un tema complejo que en estos momentos requiere trabajo y apoyo para su desarrollo

deberá ser en conformidad con la futura normativa estatal y los acuerdos alcanzados en esta cámara en cualquier caso con independencia del ámbito competencial del sistema de control de precios del alquiler privado lo que está claro es la necesidad de establecer un sistema de información y los instrumentos estadísticos necesarios para su puesta en marcha

que su grupo sí podría apoyar esta enmienda transaccional ya que como digo

y la información necesaria para que la regulación de precios pueda ser efectiva en todo caso también agradezco su disposición a intentar acordar para terminar ya que usted

mención a la emancipación de las personas jóvenes simplemente recordar que los socialistas vascos no somos ajenos a la problemática del alquiler entre las personas jóvenes de ahí entre otros muchos el programa gaztelagun

que se ve incrementado en los presupuestos del dos mil veintidós en un trece coma trece por ciento y que va a pasar a partir del dos mil veintidós a adquirir la condición

es sin duda una línea una de las líneas estratégicas del gobierno pero la emancipación de las personas jóvenes no solo es una cuestión de vivienda sino que presenta una mayor complejidad no avanzaremos suficientemente en la materia sin otras reformas estructurales que permitan salarios dignos estabilidad laboral

en la futura ley de juventud en esta cámara eskerrik asko muchas gracias

gracias señora presidenta bueno esto nosotros lo vemos como un nuevo ataque a la propiedad no existe ninguna evidencia empírica ni siquiera un modelo económico que sustente el hecho de que limitando el precio del alquiler se consigan corregir los desequilibrios en materia de vivienda saben por qué

en el país vasco hay escasez de viviendas para el alquiler y los dueños de las pocas que quedan saben lo que están haciendo pues ponerlas a la venta ante la incertidumbre

sino también en esas familias humildes que han ahorrado durante muchos años y con mucho esfuerzo para conseguir invertir en una vivienda y obtener

eso para empezar pero es que además existen muchos ejemplos de países que llevan años aplicando estas medidas y donde ya se ha comprobado que lejos de ser efectivas han conseguido el efecto contrario reducir la oferta de la vivienda y aumentar el precio del alquiler es más en buena parte de estos lugares la norma ha sido declarada inconstitucional como por ejemplo en berlín y en parís

este tipo de regulación existe desde los años setenta y actualmente se está debatiendo su derogación por su ineficacia ya que no solo ha conseguido que los precios del alquiler suban sino que para aquellas viviendas que están bajo este régimen regulado en estocolmo

en barcelona por ejemplo tras un año de aplicación de la medida los precios

en vox lo tenemos claro iniciativas como las que nos plantean lo único que consiguen es distorsionar el mercado tensionar aun más las zonas donde se pretende aplicar ahuyentar a los inversores y castigar a las familias vascas que llevan años ahorrando para invertir en una vivienda

si limitas la oferta de cualquier cosa en un mercado el precio va a aumentar si artificialmente se reduce la rentabilidad futura de los propietarios de inmuebles

por construir y no hablemos del absurdo que puede ser definir lo que es una vivienda vacía y además controlarlo

se considera vacía o no ustedes no están pensando en los vulnerables ustedes prefieren tirar de populismo y criminalizar a los propietarios como causantes de la situación a quienes expropian parte de sus ingresos mientras que además les suben los gastos de electricidad el seguro de hogar el ibi los intereses de la hipoteca la solución para bajar los precios de los pisos de alquiler

no pasa por crear programas de ayuda al alquiler que también limitan las viviendas en los que los jóvenes pueden vivir al topar el precio máximo de alquiler por lo tanto

incidían en ello y apostaban por ejemplo por convertir los locales comerciales vacíos en nuestras ciudades del país vasco en viviendas de alquiler pero ustedes no escuchan

incidiendo en el mercado privado muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

presidenta señores parlamentarios la sociedad de hoy es fruto de la sociedad de ayer y qué se ha hecho desde el gobierno vasco pues se alentaba a las familias a comprar a ser propietarios hipotecándose durante treinta treinta y cinco años para pagar esa hipoteca para conseguir una propiedad el gobierno vasco ha colaborado durante años a esto

viviendas para revenderlas a un precio inferior al de mercado y qué sucedía

y que nos tocara un piso de vpo en el sorteo de turno y esa era la única oportunidad

y así cumplimos aquella vieja premisa

y pasada de que todos los españoles tendrían la oportunidad de ser propietarios y de esta manera si te tocaba la lotería de uno de estos sorteos de vpo podías tener una vida mejor que tu compañero el de al lado al que por desgracia

y durante varias generaciones hemos creído que lo que había que hacer era comprar una vivienda invertir en vivienda y quiénes eran los que invertían en vivienda pues aquí en el país vasco eran familias que a pico y pala terminaban de pagar su primera hipoteca y se hipotecaban otra vez y volvían a comprar una segunda vivienda que les costaba una barbaridad pagar para qué

una mejor vida de mayores seguramente alquilándola o simplemente para que cuando sus hijos fuesen mayores y se independizaran no tuvieran que sufrir

entonces ahora en el dos mil quince este parlamento se aprueba una ley de vivienda y este

tiene que desarrollar una serie de reglamentos cuarenta y siete y se empieza

el canon a las viviendas vacías y entonces esto qué es pues que a todas esas personas que durante años se han comprado han estado ahorrando han estado

poniendo de lado un dinero para comprar una vivienda para un futuro mejor pues tienen que pagar diez euros por metro cuadrado si esa vivienda es declarada vacía

en el peor de los casos se expropiará esa vivienda durante cinco años para alquilarla y se puede prorrogar hasta diez años y entonces

al que tienen que alquilarla y dónde queda la ley de la oferta y la demanda si ustedes quieren influir en los precios del alquiler lo que tienen que hacer es aumentar la oferta y para aumentar la oferta tienen que invertir en viviendas públicas de alquiler

o de una vez por todas asuman completamente la competencia de vivienda en vez de tener a los ayuntamientos construyendo vpo o viviendas tasadas háganlo ustedes que para eso es su competencia saben por qué los ayuntamientos han creado sociedades de vivienda pues porque el gobierno vasco

no estaban siendo atendidos en lo que a vivienda se refiere por el departamento de vivienda del gobierno vasco entonces quedamos en que

su competencia y ahora quieren meterse a gestionar lo privado acotando los precios de alquiler

o expropiando ojo que todas esas familias a las que quieren influir son ahorradores trabajadores

de vivienda nunca ayudó y para las familias y los jóvenes que tienen dificultades para acceder al mercado de alquiler tienen que saber que este gobierno

para darle salida sino parches lo que proponen en estas mociones son parches no atacan al problema en su raíz pan para hoy y hambre para mañana

y ustedes controlarán los precios a mayor demanda disminuye o a mayor oferta disminuye la demanda y bajan los precios

para solucionar un problema crear otro problema a las personas familias

no se trata de machacar o coaccionar o amenazar a quien ha sacrificado o ha podido sacrificar mucho por tener

se trata de atender a todas las familias que demandan una vivienda a jóvenes

martínez zatón ha dicho intervenir en el mercado de manera directa es una barbaridad es una barbaridad

en el que se basa nuestro sistema económico preservar la propiedad privada

influyendo de otras maneras en el mercado y eso se llama

sin llegar a tener una economía dirigida que es a lo que ustedes quieren llegar y acabaríamos generando un problema para solucionar otro y de verdad no se solucionaría el problema porque con todos los ejemplos que se han dado en esta tribuna en otros países en los que llevan años

en eliminar esas leyes como en parís como en berlín por lo tanto lo que ustedes proponen ya se ha propuesto en otros países y no ha funcionado lo que sí funciona es

vamos a construir más vivienda pública de alquiler y así

a esas familias y a esos jóvenes que necesitan un empujón para independizarse o para tener una vivienda digna gracias eskerrik asko

empezando por el final sí lógicamente elkarrekin podemos izquierda unida apuesta por la intervención del mercado para una justa redistribución de la riqueza eso no hemos descubierto

nada nuevo y de hecho señora larrea

que entiendo que su partido defiende y

de mercado sin ningún tipo de límite nosotros sí nosotros hace años desde mil novecientos noventa y seis no estamos en ese consenso de mil novecientos setenta y ocho otra cosa es que no utilicemos las herramientas legales en vigor para mejorar la vida de la gente le invito a leer el artículo ciento veintiocho toda la riqueza del paísen sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general

ese creo que es igual de válido que el resto de es una pena los primeros artículos de la constitución tienen más valor pero este debería de tenerlo

unos artículos no sé revolucionarios comunistas o demás pero es la norma que está en vigor

para poner en marcha medidas que protejan a la gente porque no son medidas contra nadie de hecho los pequeños propietarios

lo que hacen es una parte de lo que también se hace aquí en euskadi y

y las viviendas además tienen una función social también establecida en la constitución sean de pequeños propietarios

cómo se interviene en la vivienda de los pequeños propietarios y cómo se interviene en la vivienda

una vivienda en un barrio por ejemplo en rekalde a dos mil euros el precio esa vivienda pues si es legal sí es legítimo yo tengo mis dudas entonces habrá que incentivar que por lo menos la sensibilización social hacia la vivienda aumente

no es palo y el decreto de vivienda vacía si algo podemos además nosotros criticar es que es demasiado demasiado demasiado demasiado garantista y para que cuando se movilicen

tenga competencias para regular el mercado sin problema

aprovechar que hay un marco para tener nuevas competencias en los debates sobre una ley propia se han dado se podrán dar nosotros y nosotras en función del contenido pero bueno en términos teóricos

una ley propia y además es que va a haberla va a haberla porque la propia ley

van a tener que regular y normativizar en su ámbito de competencia la regulación de los precios del alquiler y es lo que por ejemplo también a través

estamos haciendo lo que estamos intentando impulsar también en otras comunidades autónomas y lo que hemos tratado de impulsar a través de esta ley en el estado son nuevas competencias que emanan ahora mismo

la competencia para regular el mercado está en el

soberanía para los vascos y para las vascas de una manera limitada porque la ley va a ser muy garantista para con los grandes propietarios pues sí pero

gracias señora presidenta voy a ser muy breve simplemente remarcar alguna de las ideas que he expuesto anteriormente a la señora de egilaz

y de seguridad jurídica sobre todo de seguridad jurídica el anteproyecto de la ley de vivienda prevé ese sistema que va a permitir de manera jurídicamente segura controlar los precios en el mercado del alquiler

el horizonte está previsto para el año dos mil veintidós de hecho está dentro de los planes de reforma unidos a los fondos europeos así que ahora mismo lo que yo invito es a que aprovechemos esta oportunidad que tenemos vinculada a la ley estatal de vivienda como decía antes que es necesario recorrer que es necesario apoyarla

entre otras muchas cosas también clarificar cuál es el marco competencial de las administraciones y dónde vamos a poder entrar desde el gobierno vasco así que la aprobación de una ley propia de limitación de precios de alquiler en todo caso siempre va a tener que hacerse de conformidad con ese

en esta cámara así que con independencia de ese ámbito competencial creo que ahora lo importante y lo que hoy se discutía aquí o lo que debatíamos aquí

fundamental destacar es ponernos a trabajar en ese sistema de información de instrumentos estadísticos que hoy por hoy no los tenemos desarrollados

lo están haciendo que ya lo han desarrollado que de hecho el propio organismo el ine

estatal ya están trabajando en esta puesta en marcha de un sistema de información y de instrumentos estadísticos y aquí lo tenemos que hacer tenemos la competencia fiscal en las administraciones forales y es muy importante que busquemos un sistema que garantice esa colaboración

para que sin más demora pongamos en marcha este sistema de información el departamento de vivienda como digo maneja mucha información estadística pero en su mano

las haciendas forales así que es importante establecer este sistema y hoy es lo que traíamos aquí esa puesta en marcha y garantizar ya la información transparente y necesaria para que tengamos que sea eficaz ese sistema de control de precios

de dónde termine finalmente todo nuestro desarrollo legislativo que seguramente tendrá como siempre muchos ámbitos competenciales pero que de entrada

que es el que nos da la garantía jurídica por otra parte así que nada más y muchísimas gracias eskerrik asko pérez andrea

lege aurreproiektu horren la disposición final primera

que cuando habla de las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda lo que hace es modificar la ley de arrendamientos urbanos eta nik hori hartzen dut oinarri bezala

gaur egun garatzen ari garen etxebizitza politiketan jarraitu behar dugula señora larrea estoy de acuerdo con usted en que la mejor política de vivienda es la de seguir ampliando el parque público estoy absolutamente de acuerdo

efectivamente pasa por ir ampliando la oferta pública de vivienda que ya por sí misma es un elemento muy importante para el propio control de los precios del alquiler en el mercado privado cuanta más oferta pública haya los precios del mercado privado también bajarán y es un ejemplo claro que en lugares de europa donde el parque público es mucho más grande que el nuestro bueno pues los precios no son

adaptar a nuestra realidad que tenemos una oferta de alquiler muy pequeña con los precios muy altos y por eso decía también que legislando aquí

ad hoc para la situación que tiene el mercado de vivienda en euskadi y para eso es desde luego el ejercicio de nuestras competencias de nuestro autogobierno y en eso

el tema del alquiler se debe basar más en acuerdos que en imposiciones y ese debe ser siempre el camino teniendo en cuenta además que debemos respetar la ley de la oferta y la demanda

ustedes lo invaden todo odian la propiedad privada pero eso sí la de los demás siempre ocurre lo mismo su máxima preocupación es

educación privada sanidad privada esa es su única preocupación todo sustantivo que lleve el adjetivo privado por delante o por detrás ese es el problema

es algo que no han debido de entender muy bien pero que hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo nos hablaba usted de la constitución del artículo que le interesa

reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia es más este artículo goza de medidas constitucionales de protección establecidos por la propia constitución y de hecho dice cabe recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley

gracias a ver a dos mil euros en rekalde no se lo va a alquilar nadie digo eh por el tema del

o la ley de la oferta y la demanda ustedes quieren atentar directamente contra la propiedad privada los de la nueva política utilizan un concepto muy viejuno que no ha funcionado allí donde ha sido aplicado pues venezuela cuba

que se ha aplicado y no ha funcionado en los países con economías dirigidas solo han traído pobreza y sufrimiento a sus ciudadanos habla de intervenir la propiedad privada una sociedad más justa y la sociedad justa es aquella que recompensa el esfuerzo no aquella que recompensa a todos por igual sin haberse forzado de la misma manera usted también ha dicho de la constitución

quiere cambiar el orden de importancia de los artículos de la constitución o más bien quiere alterar el orden constitucional eso es lo que quiere hacer muy bien yo lo único que le puedo decir es que a nosotros nos toca

para que siga habiendo inversiones en este país y no generemos incertidumbre y lo que tenemos que hacer desde el país vasco desde el gobierno vasco apoyar y ayudar a las familias que tengan dificultades para encontrar una vivienda digna desde el departamento de vivienda ampliando el parque público de vivienda
en alquiler gracias eskerrik asko larrea

puntuka por separado

a algo que empezó a pasar a partir de mil novecientos cuarenta y seis en plena época franquista cuando

introducir en la ley hipotecaria una cláusula mediante la cual equiparaba

a los notarios de manera que y hay que decirlo claramente

por su apoyo al levantamiento militar

servicio prestado al franquismo se permitió que la simple palabra de un obispo

para decir que determinada propiedad determinado bien era propiedad de la iglesia sin ningún otro

título que acreditase que la propiedad realmente correspondía a la iglesia

la iglesia católica las jerarquías eclesiásticas de la iglesia católica con su sola palabra inscribir bienes a su nombre en el registro de la propiedad en mil novecientos noventa y ocho esto fue a más

consideraba que los lugares de culto eran bienes de dominio público no se le ocurrió pensar que podían ser inscritos simplemente por la palabra de los obispos

se aumentó esta posibilidad esta capacidad

de las jerarquías eclesiásticas a partir de ese momento también los lugares de culto podían ser inscritos en el registro de la propiedad

jabetza erregistroan entre mil novecientos noventa y ocho y dos mil quince

por la iglesia católica sin embargo sabemos que los bienes inmatriculados por la iglesia católica de manera irregular son muchos más

resulta que aquí en euskadi se inscribieron

pero sabemos sabemos gracias a una iniciativa que se aprobó aquí en este parlamento por la que se instaba al gobierno vasco a que se publicaran

desde mil novecientos setenta y ocho sabemos que aquí desde mil novecientos setenta y ocho a dos mil quince se inscribieron quinientos treinta propiedades es decir sabemos que el listado que nos ha enviado que ha publicado el gobierno de españa es insuficiente que se queda muy corto en el caso de euskadi ochenta y ocho quinientos treinta la diferencia es amplísima

hacer justicia pasa por la necesidad de declarar la nulidad de todos aquellos bienes cuya propiedad únicamente se haya acreditado mediante certificación

incautado por la iglesia católica de una manera fraudulenta y gracias además a una ley franquista que la democracia no fue capaz de derogar hasta el año dos mil quince la tarea de recuperación de estos bienes es responsabilidad de todas las administraciones públicas sin embargo y habida cuenta del enorme poder que posee la jerarquía eclesiástica no podemos delegar esta tarea en los municipios y menos aún

y la responsabilidad de enfrentarse a litigios la tarea de ir investigando una por una

es una tarea que no se puede delegar en estas instancias de hecho en la mayoría de los municipios de euskadi se desconoce cuáles son estos bienes que siempre habían pertenecido al pueblo que se pensaba que pertenecían al pueblo

es importante que este parlamento también vuelva a tomar cartas en el asunto y en este punto sí me gustaría reconocer la labor de la coordinadora ciudadana recuperando los bienes inmatriculados indebidamente por la iglesia católica que está haciendo una grandísima labor de investigación

de divulgación sobre esta materia aquí tenemos presentes a dos miembros de la plataforma

recientemente constituida antes de ayer se constituyó y que seguirán llevando a cabo en nuestro territorio esta labor como digo de investigación

reconocimiento a ellos y a ellas en definitiva con esta iniciativa lo que tratamos de conseguir

lo que es del pueblo un amigo común suele decir que la iglesia católica tiene la eternidad para defender sus privilegios

la acción de la representación política que constituye esta cámara culmina con el fin de esta legislatura

y además una manera de apropiarse indebidamente de todo este patrimonio que es del pueblo con la siguiente fórmula que se repite

las actas las notas simples del registro que tenemos tal y como he dicho gracias a aquella iniciativa que trajimos en dos mil quince y dicen así y me gusta repetirlo para que se vea que hoy en día no utilizaríamos seguramente un lenguaje tan florido

lo resumiríamos muy brevemente pero dicen poseen la finca

hay diferentes fórmulas poseen la finca descrita en plena propiedad

posesión pacífica desde tiempos inmemoriales

de ello y lo inscribe por la gracia de dios y la santa sede apostólica solicita dicha inscripción y eso era lo único que necesitaban esa era la fórmula de inscripción de todos estos bienes existiendo como he dicho en los diferentes archivos municipales

ha sido quien ha construido ha pagado con su

este tipo de patrimonio sea el que sea pero esta era la fórmula que han utilizado y que se puede leer en cada una de las actas notariales eta

sí gracias presidenta buenos días señorías buenos días también a estas personas que nos acompañan hoy

los grupos proponentes este debate que tenemos hoy aquí

legislatura pero concretamente esta deviene de la publicación del estudio elaborado

acordado en sede de comisión de justicia del congreso de los diputados en aquella sesión de cuatro de abril de dos mil diecisiete en la que se aprueba

u otros derechos reales inmatriculados a favor de la iglesia católica y efectivamente en esas

prolijo riguroso también complejo porque ha exigido coordinación había que poner en comunicación

y en ese informe señorías en ese informe está la lectura correcta

de lo que ha pasado en relación con estos bienes con independencia de que compartamos el fondo

reales propietarios y poseedores con independencia de eso el informe es el que tiene cada una de

respuestas a las preguntas planteamientos y posibilidades que se traen a debate de sus iniciativas vamos a ser rigurosos y en ese informe señorías consta esto es un problema no solamente de carácter de sentimiento la tierra del pueblo vasco está

jurídico y nosotros somos legisladores por eso quiero que sepan que como digo en ese informe consta la evolución histórica y legislativa del procedimiento de inmatriculación y también del procedimiento subsidiario

ley hipotecaria del año sesenta y uno pasando por el real decreto de desarrollo de mil ochocientos sesenta y tres la modificación de mil novecientos nueve

en la que se consigna la originaria redacción del artículo doscientos seis al que luego se le añade el apartado de marras efectivamente mediante la ley trece barra noventa y seis de treinta de diciembre

y también el real decreto que desarrolla esto

que reforma algunos artículos del reglamento hipotecario y suprime la excepción que excluye

al culto católico luego también esto establece

de fincas vigente hasta la entrada en vigor de la ley

trece barra dos mil quince de veinticuatro de junio que es la que pone fin a eso

dudas de constitucionalidad que nunca fueron resueltas en las que se planteó la posibilidad de la inmatriculación de la certificación de la iglesia católica fuera inconstitucional pero el tribunal constitucional no tuvo ocasión de

en esta cuestión también se incluye el proceso un proceso que por cierto es muy garantista

de acceso al registro de la propiedad de todos los bienes de la iglesia católica no susceptibles de propiedad privada y la consagración además

de inalienabilidad imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público recogidos en la constitución no podemos hacer aquí un totum revolutum

bienes de dominio público bienes patrimonio histórico vamos a ser rigurosos y además hay que decir que cualquier

normativamente en el caso de que hubieran accedido pueden depurarse física y jurídicamente

también ese informe nos habla del camino procesal a seguir para la recuperación que finalizaría siempre con una resolución judicial

y a la que nadie quiere acudir porque efectivamente hay que accionar ante los tribunales tienen ustedes dos días

ustedes y nosotros todo el mundo tiene dos vías o bien una acción reivindicatoria o bien

pero también existen otra serie de problemas derivados del código civil y de determinadas instituciones de muy amplio arraigo

que todos conocemos verdad pero que en fin esto es lo que hay luego también existe

del patrimonio histórico español muy importante esto también hay que leer bien las cosas y finalmente los datos obtenidos los datos obtenidos son los que son efectivamente ya se han dicho que aparecen

fincas que se inmatricularon desde el uno de enero hasta la entrada en vigor de la ley

han hecho con título eclesiástico o con un certificado distinto

de una estadística general en la que se desprenden los datos expresados

tenemos de todo y en lo que a nuestra comunidad se refiere efectivamente aparecen

o no que da igual no da igual a ver si nos entendemos pero la cuestión no es cuántas haya sino cómo se han hecho y qué vía hay para anular esas inscripciones que la hay o no depende

ahí tienen ustedes en ese informe está todo todo cuál es el estado de la cuestión

en juntas generales donde mi compañero el juntero socialista david romero fijó perfectamente la posición la parte nuclear del trabajo que se solicita en las iniciativas como bien ha reconocido el señor estarrona está hecho y por tanto

más recursos tanto humanos como económicos como administrativos para elaborar ni nuevos inventarios ni nuevos estudios

en el primer momento en tener ese informe tenemos ese informe y tenemos datos a lo que ahora lo que estamos planteando nosotros es

digamos lo nuclear para poder solucionar esto otra cosa es que sea lo que

pero lo cierto es que lo nuclear para solucionar esto es instar al gobierno de españa que es a quien le corresponde que analice estudie las posibles modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la iglesia católica por cierto señora

que tenemos ustedes y nosotros luego no veo

parte de ustedes con nosotros no porque yo creo además que con el marco regulatorio

el camino y las respuestas están en el informe y no hay más vía con independencia de que coincidamos en lo que atañe

instituciones como la iglesia católica u otras

es arreglar esto y la solución pasa por una modificación legislativa porque si queremos alternativas distintas a las del informe

pero que sí sean rigurosas el único camino que tenemos para encontrar vías para accionar con rigor y seguridad jurídica es mediante una modificación legislativa que es el impulso que se da en los estados democráticos y de derecho como el nuestro porque lo demás no

plantean en sus iniciativas que se trabajen dos caminos por un lado

y por otro lado modifiquen la legislación que se modifique la legislación cara a una posible anulación de todas las inmatriculaciones bueno con respecto a la primera vía sabemos que existen problemas problemas de envergadura

de largos procesos judiciales complejos en prueba y con incierto desenlace gure ustez nolanahi ere

hace ahora aproximadamente un año compareció la señora diputada foral de la administración pública y relaciones municipales en las juntas generales de bizkaia a petición del grupo juntero de podemos y dio una información que creemos que merece la pena tener en cuenta en lo que a esa diputación foral respecta no había ningún bien foral que hubiera sido

en su día lo mismo manifestó el gobierno vasco cuando se le preguntó

ningún ayuntamiento del territorio se había dirigido solicitando la colaboración de la diputación foral de bizkaia respecto al tema que nos ocupa

por qué no hay esas reclamaciones esas peticiones de ayuda en nuestra opinión hay tres opciones para poder aportar una explicación a esta realidad la primera pudiera ser que no es una situación suficientemente conocida como decía el señor estarrona puede ser puede ser

pudieran no estar interesados en una hipotética recuperación por la vía judicial

o la tercera que entienden que no tengan ningún derecho a reclamar los bienes inmatriculados por la iglesia en su término municipal esas tres

que también seguramente ocurra cualquiera de estas tres opciones puede operar incluso puede darse una mezcla de las tres

que puede completar lo que se había realizado desde el gobierno vasco a petición de esta cámara en nuestra enmienda lo que pedimos

estar afectadas por el contenido de ese nuevo informe informazioa badaukagu eusko jaurlaritzak legebiltzar honetara bidalitako zerrenda eta gobernu zentralak

prozedurarik hasi en su intervención decía la señora gorrotxategi que no podemos delegar en los ayuntamientos es que no se trata de delegar

para reclamar bienes de un tercero no pueden resumiendo en nuestra opinión esta primera vía de reclamación

y tenemos dudas de que finalmente sea la que se emplee

personalmente les puedo asegurar que he defendido acuerdos anteriores en esta materia y he defendido la viabilidad de esa vía valga la redundancia pero la realidad

y nos está diciendo que no se está usando incluso en algunos casos

en alguna conversación que he podido tener no con la nueva plataforma que se ha

erigido esta semana sino con la plataforma recuperando

directamente ya empezaban a desaconsejar seguir esa vía por los problemas que les he comentado

mire la primera vez que tuve que hacerme cargo de una iniciativa relacionada con la cuestión de las

y tengo que decirles que desde entonces no conozco ningún caso de reclamación

no lo conozco vamos con la segunda vía que ustedes proponen la segunda vía modificar la legislación para declarar todas las inmatriculaciones nulas

también en este caso en nuestra opinión no les vamos a engañar tenemos serias dudas de que esto pueda ser posible

no obstante no obstante la enmienda que presentamos conjuntamente con el grupo socialista busca despejar en la medida de lo posible esas dudas

sin querer entrar al aspecto jurídico de la cuestión parece que actuar legislativamente y de forma retroactiva sobre los asientos registrales pues pudiera no ser conforme a derecho el poder estar enfrentando al principio de seguridad jurídica

para finalizar voy a comentar muy brevemente la cuestión que plantea elkarrekin podemos ezker batua en torno

posibilidad de afectar al patrimonio cultural religioso de dominio público y en torno a esta cuestión

de patrimonio histórico pueden ser públicos o privados como dice como recoge la ley

en el caso de la ley vasca en este parlamento y en el congreso de los diputados y en ese momento

el debate que se nos plantea como ya han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra pues no es nuevo solo en este parlamento vasco ya se han contado creo que como

ha habido innumerables debates y resoluciones sobre esta cuestión

en otras digamos corporaciones diputaciones en toda españa también en el congreso de los diputados donde se aprobó en el año

tenían alrededor algo que curiosamente no se ha citado todavía que es la catedral mezquita de córdoba

pero el resto de argumentos y el resto de propuestas o resoluciones o sentido de resoluciones pues yo creo que era en parte ya conocido como ha dicho

la señora gallástegui anteriormente que ha hecho un gran repaso sobre lo que ha sido el íter cronológico de este tipo de iniciativas

el gobierno elaboró un informe sobre los bienes que se habían inmatriculado

los grupos proponentes o irregularmente y hombre yo creo que ya acusar de esas cuestiones si no conforme al procedimiento específico que se establecía en la legislación hipotecaria que luego también

un informe que por cierto un informe que se publicó es público

con mediación por cierto de una resolución del consejo de transparencia y una sentencia de lo contencioso por

a lo que yo voy es que la señora gorrotxategi yo por el

a todos los grupos yo creo que

utiliza este tema o este asunto como parte de ese proceso

su grupo y su partido político en otros lares de revisión de la transición de la historia reciente del papel que además lo ha confesado usted ha citado el franquismo franco aznar mucho peor que franco incluso le he escuchado decir y tal

debate o una cuestión política que tienen ustedes en este caso de revisión de la historia reciente de españa y donde bueno pues aquí hay una cuestión también colateral que es el tema de la iglesia católica sobre el aspecto jurídico pues yo creo que el resumen que ha hecho la señora gorrotxategi ha sido muy descriptivo

muy concreto muy específico yo creo que los argumentos del señor atutxa

una se solicitó la elaboración de un listado de bienes digo yendo al fondo de la cuestión se solicitó la elaboración de un listado de bienes inmatriculados

y es público por lo tanto se sabe qué bienes son y conforme a la misma legislación si existe una persona que

usurpado su derecho de propiedad o lo que fuere pues puede recurrir a la justicia a través de a través de un título jurídico válido porque aquí hay que recordar dos cosas primero una de las cosas que no le he escuchado a la señora gorrotxategi también es jurista es que las inmatriculaciones

de una autoridad eclesiástica sino que se hicieron incluyendo

ese es otro debate que me parece muy interesante que lo tengamos españa es uno como seguramente usted ya sabe

mantiene dos registros en paralelo el registro catastral pertenece a hacienda y el registro de la propiedad que lo lleva justicia y es verdad

esos dos registros en españa pero bueno el título catastral pues también es un título que contribuye a establecer una prueba suficiente para que se inscriba un determinado bien inmueble en el registro de la propiedad

poseyendo una serie de bienes que lo que hizo fue proceder a su inscripción que luego se puede establecer aquí un debate jurídico sobre si más si menos bueno pero yo creo que el ordenamiento jurídico sobre todo tal y como está en estos momentos permite que si alguien siente o alguien percibe o alguien padece sobre todo en su patrimonio una agresión en este caso precisamente porque se ha visto desposeído

y que perfectamente ese tribunal corrija la posible inscripción que haya realizado un registrador por eso digo que existe en este momento una vía jurídica claro yo he escuchado en el discurso inicial de la señora gorrotxategi pues sí que he escuchado algunas frases que las tengo por aquí apuntadas claro decía usted no es que la iglesia como tiene la eternidad bueno pues es posible no la verdad es que hay determinadas ideologías que sí que parecen más

pues hombre efectivamente yo creo que por eso

lo que yo creo que el debate de fondo aquí se ha hablado de que ha habido unos bienes que han sido injustamente vamos a decirlo así injustamente

era la institución que los llevaba poseyendo de forma pacífica durante mucho tiempo y en la que por otra parte porque el propietario tiene unas obligaciones también

muchos edificios que tienen como ustedes saben pues una serie de gastos anejos que son importantes pero claro

su legítimo y quién es el legítimo propietario si no es la iglesia católica el pueblo en general claro ustedes aquí qué están planteando si están planteando una reforma de la legislación

instar procedimientos expropiatorios eso es otra cuestión si por razón de utilidad pública se quiere expropiar un bien esa es otra cuestión que es lo que se hizo en francia por cierto usted ha citado países europeos en general hay algunos matices en el caso francés pues se siguieron en su momento a principios del siglo pasado unos procesos de expropiación

con ciertos episodios tristes que han sucedido por eso no entiendo muy bien

hay una protección jurídica de la persona que pueda esgrimir un título jurídico válido contra el que haya podido

si usted lo que está planteando es un debate ideológico sobre el papel de la iglesia durante la transición como creo que he visto que se

vislumbraba en su discurso inicial ese es otro debate distinto por eso creo que las explicaciones que también han dado hoy los portavoces del gobierno

y sobre todo me han parecido perfectamente válidas por eso no entiendo la enmienda que presentan los dos grupos que sustentan al gobierno no porque si lo que se le pide al gobierno vasco es que solicite al ministerio de la presidencia el listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica

ya existe ese informe no sé si están pidiendo que se haga una actualización y tal algún grupo decía no y que se permita que lo que se inste

digamos recuperar bienes que estén ilegítimamente en manos de la iglesia y que son de la corporación local oiga pues si existe eso

para que los letrados de la diputación además hay partidas presupuestarias específicas para asistencia jurídica de los municipios que no tienen los medios suficientes para hacerlo

y ya lo que sí me extraña más es el segundo punto

donde se insta al gobierno a estudiar modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente hombre yo creo que la esencia ya está en nuestro ordenamiento

era bueno ya está en nuestro ordenamiento ya existe un procedimiento en este sentido y sobre todo como bien ha dicho el señor atutxa los procedimientos en este caso

pues también tiene sus complicaciones y ahora hacer una norma que venga a revisar toda esta cuestión

va a suponer mucho más problemas va a suponer muchísimos más enjuiciamientos de cuestiones va a aumentar el número de situaciones de inseguridad

porque la situación va a seguir con los poseedores que están siendo hasta ahora los mismo

que ha marcado ha sido un poco complicado también eh pero bueno yo la he podido seguir en todo caso sea cual sea esa cronología

y que no podemos negar y que es la base de todo esto y es que en el año cuarenta y seis la legislación franquista concedió la capacidad

a los obispos y eso es un hecho más allá de toda cronología más allá de todo íter normativo más allá de cualquier otra cosa

de recorrer lo cierto es que hubo un momento en el que en este país a los obispos se les dio la capacidad de decidir decir qué era suyo

sin que nadie se lo pudiera rebatir porque se les concedía esa capacidad de ser fedatarios públicos claro

porque eran los obispos ellos por ser quienes eran quienes podían determinarlo y

a las páginas de la iglesia católica cuando hablan de las inmatriculaciones

el título habilitante de esta propiedad es que es que de toda la vida de siempre

erigir edificios y bienes concretos

lo estaba haciendo para que fuera la iglesia católica quien gestionara esos bienes

con el título de propiedad claro si aceptamos esa premisa

que la iglesia católica cuando acudía a registrar los bienes pues tenía cierto título habilitante

es una cuestión ya de principios es un poquito como si aceptáramos la premisa de los reyes absolutos que dijeran o de los reyes feudales antes mejor dicho que decíamos que las tierras eran suyas porque sí porque eran suyas

difícil de aceptar y en todo caso yo creo que no podemos aceptar un estado aconfesional un estado

pensar que haya personas que por su jerarquía eclesiástica tengan la capacidad

de actuación indebida de inscripción de los bienes indebidas claro está todo hecho no no está todo hecho

que proporcionó el gobierno de españa es de mil novecientos noventa y ocho y como he dicho antes en euskadi por ejemplo pero

antes del año mil novecientos noventa y ocho con lo cual necesitamos

todos esos datos ya desde el cuarenta y seis porque ya entonces consideramos

incluye no solamente un bien exclusivamente una iglesia sino que

el campo de fútbol de escoriaza la plaza del pueblo donde están los columpios donde juegan los niños de escoriaza es propiedad de la iglesia católica la giralda de sevilla es propiedad de la iglesia católica el buen pastor es propiedad de la iglesia católica

claro la iglesia católica como propietaria puede decidir también además cobrar entrada

mientras que después la manutención los trabajos de conservación corresponde al dinero público o a veces cuando las administraciones públicas no tienen dinero para invertir

vecinos y vecinas de un pueblo por eso es necesario saber cuáles son todos esos bienes que si indebidamente consideramos que indebidamente fueron inmatriculados

y qué inversiones públicas y privadas se han producido para el mantenimiento de esos bienes y a partir de ahí a partir de ahí tomar las decisiones también lógicamente normativas necesarias porque y señor gordillo

jurídicos para revertir la inscripción de un título aparte de que solo hay dos meses para revertir esa inscripción en teoría pero no es tan sencillo

lo primero que hace falta es conocer cuáles son y es un dato que todavía no sabemos por eso es importante que el gobierno

e impulse al gobierno de españa a hacer lo suyo para que para empezar tengamos el conocimiento suficiente y a partir de ahí a arbitrar las medidas normativas de cambio necesario eskerrik asko

un tema bastante apasionante y que tiene muchos puntos de vista tanto históricos como jurídicos y que podríamos

bastante tiempo debatiendo sobre los mismos hay una preocupación lo primero constatar una preocupación porque el hecho de la inmatriculación de manera indebida

chirriar y a mí lo que me chirría es que no le parezca indebido que se hayan hecho una serie de enajenaciones de algunos inmuebles o de patrimonio en base a una ley franquista en mil novecientos cuarenta y seis es decir unas enajenaciones unas inmatriculaciones basadas en una ley de un régimen dictatorial como ha padecido el estado español durante décadas eso sí que me llama poderosamente la atención o incluso me preocupa me preocupa

comentaba la señora gallástegui que yo había reconocido que

pero se han llevado a cabo las que el parlamento de alguna manera mandató a los registros y al decanato de registradores

se han llevado a cabo y no lo digo yo no lo digo yo lo dice la señora garamendi cuando esta misma legislatura y en respuesta en marzo de este mismo año nos dice que su departamento el departamento que dirijo yo no tiene constancia de que el gobierno vasco haya puesto en marcha ninguna iniciativa con posterioridad a la remisión al parlamento vasco

de ese no listado porque no es un listado lo que tenemos entre manos

es una serie de documentos los documentos originales de los registros que tenemos pero nadie ha trabajado sobre los mismos no hay un listado cuántos son cómo son qué inversiones públicas ha habido en esos patrimonios privados que también disponemos de esa información en qué año fueron a través de qué obispo fueron a quién pertenecería o quiénes serían sus legítimos

de ese bien y eso es un poco lo que se planteaba y se solicitaba al gobierno

un listado en el cual pongamos negro sobre blanco de qué estamos hablando

tuvo que debatir por primera vez esta cuestión en las juntas que no tenía conocimiento de ningún caso que

a reclamar claro es que cómo va a tener conocimiento si la gente no sabe ni que esto existe si la gente no sabe ni que esto se ha dado

cómo va a haber pueblos que se planteen reclamar algo si no saben ni que tienen posibilidad o capacidad de hacerlo o cómo indebidamente la iglesia católica en este caso se apropió de ellos algo que pertenecía al pueblo y que en los archivos así queda constatado evidentemente no hay peticiones en este sentido

veníamos a plantear también en nuestra proposición no de ley y hablamos de la creación para eso de una comisión especial pero con el fin de estudiar el tema de estudiar

sobre todo pero también con ayuda de las administraciones que se han volcado y eso es hoy lo que le decía que hasta la fecha y hasta antes de ayer que se presentó la plataforma

dando pasos en el buen sentido de ir

a un proceso de posible recuperación ya veríamos si por vías judiciales individualizadas o con un cambio legislativo

la más lógica y la que más visos de poder llegar a buen puerto tenga

para eso tendremos que saber de qué estamos hablando y para eso también las propias administraciones tendrán que saber cómo pueden atajar esta cuestión y si merece la pena o no merece la pena y entiendo que habrá casuísticas diversas porque estamos hablando eso en hego euskal herria de más de dos mil quinientos bienes inmatriculados indebidamente

todo han sido avances en este sentido y en la materia que nos ocupa pero sin embargo hoy constatamos una especie de retroceso porque

a liderar un poco porque alguien tiene que liderar en este país porque si no

y quién se pone a coordinar entre las administraciones esta cuestión

especial con el gobierno vasco las diputaciones de los territorios históricos también los representantes de eudel

no se puede ir vía judicial porque esto es un proceso larguísimo que además podemos tener varapalos judiciales que sean contrarios a nuestros intereses de recuperación

no ha existido eso y eso es lo que hoy constatamos que de alguna manera algo a lo que hasta la fecha había mostrado disposición este gobierno hoy no lo hace por lo tanto por eso digo que creo que esto es un error

no hemos tenido demasiado tiempo para hablarlo debidamente y para poder llegar

el itinerario jurídico que este asunto lleva porque creo que el trabajo digamos nuclear que es el que tiene que ver con la relación de las fincas inmatriculadas

porque efectivamente habrá algunas que puede que estén indebidamente inmatriculadas y otras que no

su intervención señora gorrotxategi la inmatriculación no es nada más que la primera inscripción en el registro de cualquier bien susceptible de registra yo coincido con usted en que

es una ley franquista pero no solamente lo es por lo que dice usted lo es fundamentalmente porque esa ley

con el estado con la provincia el municipio y las corporaciones de derecho público

de aquel cuando carezcan del título

escrito de dominio podrán inscribir los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada

en la que se expresara claramente el título de adquisición o el modo en el que fueron adquiridos

el problema es que efectivamente con posterioridad la ley del noventa y seis y la modificación reglamentaria del noventa y ocho

diocesana se puedan inscribir obras nuevas mejoras

etcétera y ese es el problema en realidad pero el problema es fundamentalmente jurídico que es una ley franquista ya lo sabemos y que franco no acabó cuando se murió también lo sabemos y que los pueblos de euskadi

las propiedades públicas de euskadi puede que haya alguna que esté indebidamente en las manos incorrectas también pero el íter jurídico usted lo sabe como yo es el que es y es un íter jurídico que no ha sido contestado de ninguna manera por ninguna ley constitucional por mucho que usted lo diga señora gorrotxategi porque entre otras cosas además aparte de que no hubo ocasión

en los artículos de la ley orgánica del tribunal constitucional que usted conocerá como yo que son el treinta y ocho y el cuarenta y uno que no permiten

ni la aplicación hacia atrás

usted lo sabe perfectamente igual que yo la cuestión del informe yo creo señor estarrona coincido en que efectivamente

cómo conseguir recuperar los bienes que en su caso hayan sido indebidamente inscritos y que estén y cuya propiedad

en las manos equivocadas o en las incorrectas en este caso la iglesia católica pero cualquier otras porque

con independencia de lo que podamos estar discutiendo hoy y habrá que recuperar esas cosas

con el material jurídico que tenemos en nuestras manos lo tenemos difícil y hemos pensado que

gastar recursos económicos administrativos humanos personales crear comisiones

analizar una modificación legislativa que será la única que nos permita agilizar y flexibilizar los procesos para poder en definitiva conseguir que lo que no es suyo no esté

equivocadas es simplemente eso y eso a mí me parece no solamente en fin me parece un mandato muy importante

a quien tiene la competencia para hacerlo y por lo tanto me parece un avance bastante mayor que crear una comisión me va a perdonar eskerrik asko

bueno señor estarrona la segunda vía evidentemente es la menos costosa desde el punto de vista humano y económico

no me siento capaz de medir las consecuencias jurídicas

se pudiera hacer o se viera factible hacer esas modificaciones

lo que estamos queriendo hacer es demostrar una hipótesis dedicar recursos materiales y económicos a

que nos ocupa araba bizkaia y gipuzkoa seiscientos catorce hipótesis y le voy a decir una cosa que personalmente conozco bien los archivos pueden ser muy ingratos muchas horas de dedicación

puede ser puede ser encontrar un documento de propiedad

que pueda reforzar vamos a decir

que sobre una propiedad tenga una determinada institución no es fácil y es seguro porque estamos intentando encontrar un documento que no sabemos si existe que lo desconocemos

no lo sabemos señora gorrotxategi yo en esta cuestión le pediría

al margen cuestiones ideológicas en las que no vamos a avanzar porque no vamos a llegar a unos acuerdos en el ámbito

macro y que seamos más pragmáticos a día de hoy no hay peticiones de ayuda por parte de las instituciones por los motivos que sean los he dicho en mi primera intervención no los voy a repetir hasta donde este parlamentario les puede

descartando esa primera vía posible de recuperación para acudir a los tribunales y se posiciona por la vía de los cambios legales vale vía que en nuestra opinión puede tener o tendrá el recorrido que tenga pero

el acento básicamente esta es la realidad

bueno al final lo que ha quedado claro en este debate es que el debate que se pretendía suscitar era otro

enjuiciamiento del franquismo el tema de la confesionalidad del estado

no tengo inconveniente en debatirlo pero hombre me gusta centrarme un poco en los términos otra vez más en su réplica no ha comentado inmatriculaciones que se hicieron se hicieron mediando una certificación catastral que es otro título es que no es solamente con la posesión inmemorial que ya es pero en todo caso la posesión inmemorial admite una prueba en contrario es decir

puede discutirlo y puede plantearlo decía el señor estarrona es que es importante conocer bueno hay un listado de bienes no pero queremos más pero conocer quién no los particulares que se han visto afectados oiga pues si un particular una persona se ve afectada en un bien

cree tener algún tipo de derecho hombre yo creo que la persona lo conoce perfectamente yo no sé si tienen mucha experiencia

en los pueblos todo el mundo sabe hasta dónde llega la linde de tu tierra y la otra todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe con lo cual no lo entiendo

decía la señora gorrotxategi es que hay espacios públicos que son propiedad de la iglesia y que tal

y no es que es un espacio que va a utilizar el consistorio tiene que utilizar

expropiar ese terreno mediando también un justiprecio por lo tanto yo creo que sí que hay unas respuestas que ordenamiento jurídico pero luego la conclusión oiga es que el informe del gobierno de españa aquí está

concluyó que la iglesia no inmatriculó bienes a su favor sin mediar título

es que no era solamente la declaración de ser un bien que inmemorialmente había poseído la iglesia católica es que vuelvo a insistir me dio otro título que por cierto es el que se utiliza también habitualmente para iniciar procesos

que es el certificado catastral por eso lo que insisto y ya con esto acabo es que aquí lo que parece es que había otro debate

obsesión particular que es enjuiciar la historia reciente el franquismo mire ningún inconveniente en que tengamos un debate sobre esto cualquier día vendrá aquí a proponer que se declaren nulos todos los matrimonios celebrados en el franquismo porque los celebró también la iglesia católica pero

y votaremos por tanto en contra muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna